legebiltzarkideok la señora celaá ha hablado de

y decir que cuando entramos en un colegio no debemos sentirnos que entramos en el túnel del tiempo

dije voy a ir a un par de meses o tres que está en marcha

y sentí que entré en el túnel del tiempo porque la profesora que estaba

era la profesora que yo tuve en quinta egb sentí eso pero me

que era lo que quería decir no estaba haciendo una crítica me llevé una

hacia las nuevas tecnologías y el esfuerzo que estaba haciendo ya con cincuenta y tantos años

era un túnel del tiempo quería utilizar la metáfora para reivindicar el esfuerzo que han hecho todos los profesores para

a las nuevas tecnologías y de ahí la importancia de la formación de los profesores y reconocer el esfuerzo que están haciendo quería reconocer y utilizar

hablar un poco sobre la evolución que han tenido las tecnologías

de la comunicación y de la informática en euskadi euskadin teknologiek

que se diseñó en un momento concreto que se diseñó en madrid sin tener en cuenta las particularidades vascas

el uso de las tics en los hogares no era el mismo que en

se hizo en un momento de recursos financieros con una tecnología determinada un entorno comoel que he

que empujaba a pero bueno lo que creemos que realmente en este momento hay que hacer es evaluar el programa adaptarlo

intentar alcanzar unos objetivos que en nuestra opinión tienen dos pilares gure ustez iktn inguruan

en las capacidades esenciales que nuestros alumnos han de desarrollar y

estas capacidades que vienen últimamente definidas desde europa como pueden ser la comunicación rápida y fluida capacidad

una competencia matemática y básica en ciencia y tecnología

que hay que trabajarlas mucho ya desde gaia el cluster de la informática y electrónica nos están advirtiendo del poco atractivo que tiene para la juventud vasca el entorno tecnológico

en europa va a hacer falta más de un millón de programadores

así como en el mundo de la tecnología en el entorno de la robótica de la automatización etcétera para hacer que la enseñanza de las tics sea más atractivo y no sea como decía un profesor que

de oficina con un enfoque poco adecuado creemos que se debería pensar en un programa en el que la computación

más ágil más atractiva de tal forma que chavales de dieciséis años sean capaces de programar un sudoku o a los dieciocho sean capaces

importantes en este sentido y para terminar voy a mencionar cuatro frases en este aspecto que mencionan señores que tienen bastante relación con todos nosotros porque lo llevamos encima de alguna otra forma todos los días

que todo el mundo en el país debía saber programar un ordenador porque te enseña a pensar y muchos por lo menos no todos

y su creador dice eso bill gates que es el que creó los ordenadores que tenemos

nuestro escaño dice que aprender a escribir programas expande tu mente

crea una forma de pensar que es interesante para todos los aspectos de la vida

habla que si tú quieres descubrir los secretos del universo o solo en una carrera profesional del siglo veintiuno la computación básica es un perfil

negroponte que era el que promovía la

decía que programar nos enseña a pensar sobre el pensar y el compilar

sí señor etxeberria ya que usted se ha puesto elevado pues mire kenneth clark que escribió todos

se fundamentaba en la permanencia en la continuidad de la cultura nosotros nos hemos encontrado con planes tales como plan premia

y los hemos seguido la permanencia genera cultura en el tiempo genera civilización esto es lo que hemos venido haciendo

tiene el sistema educativo vasco una virtud que no tienen otros tanto

porque hemos venido construyendo sobre lo existente en la mayoría de los casos y esto tiene una importancia capital no es mala herencia la que recibe este departamento de educación ochenta mil ordenadores tres mil seiscientos aulas digitalizadas

el tema eskola dos punto cero que sigue cataluña también es decir

las diecisiete comunidades autónomas de una manera o de otra en una proporción u otra en cataluña los padres y madres deciden que quieren llevarse el ordenador a casa entre otras razones porque el gobierno catalán es decir la generalitat

a cada familia una determinada cantidad una cuestión que aquí no se hizo es decir porque la decisión tomada por el gobierno vasco fue la de

a todos a todos los centros y a cada niño de quinto

en centros públicos como en centros concertados por estar sostenidos con fondos públicos por tanto la decisión aquí fue la de aportar proveer

sin coste alguno para las familias porque por mucho que digamos que los hogares vascos tenían otro nivel de desarrollo en la tecnología de la información etcétera desde luego si usted lo compara con cataluña por ejemplo no es ese el caso

por tanto sin embargo aquí tomamos otras decisiones y sabe usted por qué tomamos otras decisiones porque actuamos de manera absolutamente autónoma

este no fue un plan el que aquí se propuso y el que aquí se aplicó diseñado en madrid fue un plan eskola dos punto cero que efectivamente surge en un momento en el que el gobierno de españa decide aportar la mitad de los recursos económicos y como no

o es que el grupo parlamentario nacionalista vasco no ha conciliado

esto fue lo que hicimos traer recursos a euskadi el diseño fue absolutamente propio

las familias no quisieron llevarse los ordenadores a casa con bastante sentido común por cierto y los ordenadores se quedan en los centros

la desconocía porque no tiene por qué estar acercado absolutamente a cada uno de los extremos esta es la razón por la cual el diseño fue primero propio absolutamente propio ya desde el principio se aportan se proveen fondos recursos para la creación de materiales propios

incluida cataluña lo que se hace es digitalizar los libros de texto aquí no aquí generamos materiales propios por un millón de euros por tanto fíjese usted

y si la decisión era autónoma en fin yo no quiero más que sencillamente

y desde luego hicimos las mediciones técnicas necesarias y las aportaciones científicas fueron la de que efectivamente el riesgo era mucho menor que la utilización de un móvil por lo tanto no había

tenemos wi fi en nuestros aeropuertos en nuestras plazas de pueblo en nuestras casas y en todos los sitios pero voy a concluir simplemente con esta idea de la permanencia que nos importa tanto porque por eso hemos llegado a una transacción creo yo salvo que la letra sea falsa nos importa la idea de la permanencia y me parece que es un trabajo

fíjese usted no solamente lo decía newton cuando decía somos capaces de ver más lejos porque nos aupamos a hombros de gigantes sino que lo decía hasta el poeta git cuando decía realmente

todas ellas reciben la belleza de aquellas que las precedieron

que debiera iluminar todo lo que venimos haciendo en educación vasca y por lo tanto yo les animo a que realmente la transacción que hemos encontrado hoy no solamente sea letra vacía sino
auténtico sentido auténtico talante para seguir adelante gracias eskerrik asko

labur labur me da la sensación he estado escuchando a la señora celaá

que teníamos que hacer justo lo que ella no hizo esto es

ordenadores que habían hecho un esfuerzo en traer recursos de madrid pero ese esfuerzo no se ha realizado ese esfuerzo no ha terminado de realizarse porque todavía se están picando a veintiuno millónes en el concierto económico a cuenta de la eskola dos punto cero entonces se ha hecho un esfuerzo

siendo presidente socialista con una secretaria de educación socialista

especifica claramente cuál es el tratamiento que tiene que tener todas aquellas aportaciones que vengan por debajo de la ley orgánica de educación pero en esto momento nos encontramos con veintiuno millónes

entre madrid y euskadi entonces tenemos ochenta mil ordenadores pero tenemos

de deuda nos ha hablado también

quería plantear cataluña como una opción yo creo

que el mayor handicap que tiene eskola dos punto cero en esto momento es que el alumno no lleva

el elemento tecnológico que le estamos dotando como herramienta transversal

en todos los aspectos en los que él se va a relacionar con el colegio porque se relaciona en casa los padres se pueden relacionar con los profesores etcétera no lo está llevando por ello porque

movimientos hay iniciativas en ese aspecto que una de ellas que he mencionado que como puede ser la virtualización de los escritorios de los alumnos de tal forma que el escritorio que se puede utilizar en el colegio se puede utilizar en casa

en casa iniciativas de dotación por parte de las editoriales

ofertar en vez de una serie de libros de texto al mismo precio poder ofertar cierto libros de texto en un dispositivo electrónico

en este momento un tablet se puede en el mercado se podría conseguir por cincuenta y cinco euros cosa que es lo que cuesta un libro de texto

por tablet que cuestan cincuenta y cinco euros que es lo que puede costar un libro de texto

alguno más mi hijo señora celaá bueno mi hijo no voy a decir lo que nos ha costado en la factura los libros del mi hijo son bastante más de cincuenta y cinco

y luego en cuanto a mantener

en el sistema educativo vasco estamos de acuerdo cuando he hablado con usted siempre le he planteado los trabajos se sigan haciendo de una forma evolutiva bilakaera bat

todas las iniciativas que sean en una forma evolutiva creo que no puede ser de otra manera pero

en alguna ocasión en la que quizás

no es vaya a decir la mayor preocupación porque estaría mintiendo pero una

dos punto cero y creo que no es un

los que sabemos un poquito de tecnología sabemos que todo aquello que tenga un dos punto cero cuatro años en el mercado es que está obsoleto tiene que seguir evolucionando

integrándose en otro sistema o de la forma que sea

guk izana esaten duguna o el nombre edo izena nosotros creemos que

el nombre al objeto o al proyecto en cuestión y eskola dos punto cero en mi opinión pues como todos los nombres tecnológicos y más los terminados en dos punto cero tres punto cero o uno punto seis

como último punto del orden del día de este pleno desde el grupo popular presentamos una iniciativa

de euskadi en lo referente a la implantación de seguros agrarios en todo el ámbito agrario tal y como dice

y donde dice exactamente que el departamento de la administración general de la comunidad autónoma del país vasco competente en materia agraria establecerá

precisos concernientes a los seguros agrarios a efectos de conseguir los siguientes objetivos la implantación y el desarrollo de las líneas de actuación

modalidades tales como el seguro de instalaciones y construcciones destinadas a la producción agraria una actuación integral en las explotaciones agrarias el fomento de un seguro específico contra incendios forestales y el apoyo a la suscripción de seguros de responsabilidad civil en el subsector forestal señorías en esta comunidad autónoma podemos decir que es la única comunidad donde no existe un plan de seguros agrarios combinados de riesgos

de españa donde desde el año mil novecientos setenta y ocho existe una ley para ello y su posterior reglamento en el año mil novecientos setenta y nueve y que año tras año se dota económicamente

con un plan de seguros anual como les decía en nuestra comunidad autónoma esto no se aplica y eso significa que nuestros productores no reciben de este gobierno ninguna ayuda

cosa que sí sucede en el resto de españa en el resto de comunidades autónomas

años hay que decir que las diputaciones en sus planes de ayudas al sector agrario sí contemplan una pequeña línea de ayudas a la contratación de seguros agrarios pero es necesaria la implicación de todas las administraciones competentes y este gobierno

pero desde este gobierno vasco y principalmente desde el grupo nacionalista vasco que ha gobernado pues casi los treinta años y cuando no ha estado en el gobierno

asuntos nunca se ha mostrado el más mínimo interés por trabajar por la implantación de seguros del sector agrario en la comunidad autónoma y así ocurren hechos de fenómenos meteorológicos adversos y es cuando nos alarmamos y ocurre como el último mes de

importantísimos en rioja alavesa y solo estaba asegurada

de la producción afectada por eso les decía que esta iniciativa es muy sencilla cumplamos la ley señores una ley aprobada en diciembre de

ya sé que acaban de empezar ustedes a gobernar pero puesto que parece que otras cosas no tenemos

y consenso para entre todas las administraciones competentes y los sectores llevar y elaborar un plan de seguros para la comunidad autónoma

de productores y explotaciones del resto de comunidades autónomas y del resto de españa

tienen una ayuda del gobierno central para poder complementar los seguros que contratan cosa que no ocurre ni en álava ni en bizkaia ni en gipuzkoa en álava en una parte

para la promoción o para la implantación de los seguros en el sector

la ayuda de la diputación incide por el escaso volumen de contratación de seguros que hay y por

esta comunidad autónoma este gobierno no hace ningún esfuerzo es decir cero esfuerzos en nuestra iniciativa además pedíamos que la ley de presupuestos

decir que a esta iniciativa se han presentado enmiendas upyd presenta una enmienda de adición

que debe contener dicho plan quiero decir que creemos que

de ese plan de seguros pues se debe acordar entre aquellos que participen en la elaboración las administraciones competentes los sectores implicados y los agentes

sectoriales del sector agrario eh bildu ha presentado una enmienda y

viene a decir que se desarrolle la ley lo que a mí me ha sorprendido de la enmienda

que consta de cinco apartados y habla

el desarrollo de la ley de política agraria se acordará con los representantes de los campesinos y campesinas y este término lo repite en los cinco

término que no es utilizado en el país vasco ni ha sido utilizado nunca y le puedo decir que yo que procedo de una

de toda la vida de generaciones antiguas

tal vez piensen que les estoy insultando porque es un término que no se usa para nada

y les llama campesinos y campesinas pues probablemente

por lo tanto a mí esta modificación en el término de eh bildu me sorprende no sé si esta es una nueva deriva ya no solo asumimos las políticas bolivarianas sino que también asumimos el lenguaje y francamente yo creo que esto no representa a nadie a nadie del sector primario del país vasco por lo tanto me sorprende este término cosa que han corregido en la enmienda de transacción que han presentado el grupo nacionalistas vascos

y campesinas ya son explotaciones y son otras cosas

una enmienda que vuelve una enmienda que me ha retrotraído a argumentos de hace más o menos diez años de ahí para atrás en esta cámara una enmienda que vuelve a pedir y

su negativa a apoyar una iniciativa en base a que la competencia pendiente en materia de seguros agrarios la competencia está pendiente como le decía argumento antiguo

acordar recurren a lo de siempre cosa que se contradicen porque luego realizan documentos y hace poco he visto uno del departamento donde dice tengo competencia exclusiva en la materia

yo creo que tampoco se les ha transferido nunca la competencia en asuntos exteriores y sin embargo ustedes han creado embajadas con una disponibilidad económica desbordante

si ustedes tendrían interés lo harían y en estos treinta años ustedes han negociado muchísimas competencias con los distintos gobiernos que han pasado por el gobierno

en ninguna iniciativa ustedes les interesa tener colgando determinadas

tener ahí la matraca para darle a la manivela cuando les interesa y si esto no lo han negociado es porque no han tenido

el grupo socialistas ha presentado una enmienda que complementa la iniciativa que hemos presentado y que con la enmienda del grupo socialista

esta es la iniciativa que tenemos en manos

esperamos al segundo turno para que nos explique el

del grupo popular que creemos que es mucho mejor para el sector primario eskerrik asko lópez de ocariz andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan

gracias presidenta octavo punto último punto del orden del día un enunciado que resulta un poco

como todos los temas que vienen aquí pues tiene su interés se ha explicado ya un poco la razón de ser de los seguros agrarios se ha explicado un poco sus antecedentes

se ha hablado también las iniciativas que ha habido yo me voy a centrar básicamente

la que hemos suscrito nuestro grupo con el partido popular y la que ha suscrito el partido nacionalista con bildu en primer lugar decir que efectivamente nosotros en nuestra enmienda planteábamos que todo esto se dirima en el consejo agrario y alimentario de euskadi y en la comisión que es un órgano creado

marzo del dos mil doce y que es un órgano previsto en la propia ley y que está concebido para diseñar las políticas agrarias nos parece que es el lugar donde deben de concebirse esas cosas por eso aunque el artículo ochenta y uno no lo dice el partido popular hace referencia a las diputaciones efectivamente y las diputaciones junto con las organizaciones

pues que participen en la elaboración de ese plan de seguros agrarios combinados que como se ha dicho carecemos de él a diferencia de otras autonomías la transacción que hace el partido nacionalista vasco con bildu no la hemos suscrito no porque estemos en contra no tenemos nada que decir en contra

es decir digamos que su respuesta a la misma

dice absolutamente nada dice eso sí una cosa importante contra la que tampoco podemos estar en desacuerdo y es que se transfiera la cuestión referente a los seguros agrarios lo que pasa es que sobre el tema de las transferencias pendientes a los socialistas y desde luego a este parlamentario que habla

nos parece un poco sarcástico porque en la legislatura pasada tuvimos ocasión de ver cómo en un tema tan trascendente como la transferencia de políticas activas de empleo después de décadas pendiente la misma el partido nacionalista vasco en la oposición

de auspiciar su vuelta aquí por lo tanto entendemos que no es necesario instar a españa el partido nacionalista vasco en cualquiera de esas reuniones discretas

que se traiga aquí esa transferencia y por lo tanto no nos parece que eso sea

manos del partido nacionalista vasco llevar a cabo esa transferencia si así lo quiere por otra parte

de bildu que nos planteaba una fórmula que es desconocida que son digamos las entidades mutuales de agricultores ganaderos propietarios de montes bueno pues no es tan desconocida señor lazarobaster porque eso está recogido en el artículo treinta y nueve

la ley ochenta y siete barra mil novecientos setenta y ocho que es la ley que regula los seguros agrarios combinados y se dice además

precisamente este tipo de entidades son figuras a auspiciar y a fomentar o sea que no tiene nada de desconocido por lo tanto como digo

la transacción a la que llega partido nacionalista con bildu creemos que salvo la

que perfectamente pueden llevar a cabo cuando quieran así lo ha demostrado con asuntos de más por lo tanto no nos vamos a oponer a ello como digo pero no nos parece que aporten nada nuevo lo que sí creemos es que la iniciativa que aquí trae el partido popular en primer término de llevar a cabo la realización de un plan de seguros agrarios en colaboración con todos los agentes interesados eso es lo que realmente

pues llevar a cabo pues la dotación presupuestaria correspondiente para hacerlo así y es eso en lo que estamos y dada la hora y que el tema no es tan apasionante

legebiltzarkideok arratsalde on tengo mucha presión es el último punto del orden del día es un tema árido como pocos y desde primera hora de la mañana me han dicho que sea corto para que todos podamos ir de aquí pero con lo que se ha dicho

que le dedique el tiempo que yo creo que es el oportuno aunque ustedes puedan llegar tarde a asuntos

se dice textualmente en la ley que el departamento establecerá acciones y desarrollará los instrumentos precisos concernientes a los seguros agrarios a efecto de conseguir los siguientes objetivos a partir de ahí pasa a enumerar una serie de ellos

todo ello está echo seguramente con la conciencia de que se trata de una materia no transferida sé que esto molesta

siendo una de las materias incluidas ya por unanimidad de este parlamento en julio de mil novecientos noventa y uno hasta la fecha

que está residenciada en la comunidad sino que sigue ejercitando esa competencia en todo el estado en base a otros títulos competenciales

si bien desde el punto de vista económico supondría en este caso una duplicación de funciones por parte de euskadi

podemos ejercer la competencia nadie nos impide hacerlo eso es cierto pero a parte de la duplicidad

requeriría de un esfuerzo presupuestario extraordinario cuando lo más lógico

lo que sería lo lógico lo constitucional y lo justo de tal modo que ha día de hoy la situación en la que nos encontramos la podríamos resumir de la siguiente manera por una parte existe un programa de aseguramiento de las producciones agrícolas pecuarias y forestales mediante el seguro agrario combinado que presta la administración general del estado a través de enesa la

por otro lado las diputaciones forales gestoras de la competencia de seguros en la comunidad autónoma vasca

de seguros del ministerio con lo que se produce una segunda capa subvencional sobre el mismo objeto pero por otra parte como ya he dicho la comunidad autónoma ostenta competencia en esta materia derivada del propio estatuto de autonomía y un mandato de la ley de política agraria y alimentaría para establecer acciones y desarrollar instrumentos

lo que la ley no dice es cuáles son las acciones a realizar entendiéndose que lo que se pretendía era ser precisamente amplio para abordar en cada momento lo que se entiende prioritario si a día de hoy con las competencias

alguien pretende que el gobierno vasco presupueste una subvención para el plan de seguros

aportando una tercera capa de subvenciones a lo que establece el ministerio español o suplementar con fondos presupuestarios a las diputaciones forales

incrementar el presupuesto gastar más dinero en el presupuesto del gobierno vasco para incrementar los presupuestos forales y que el estado no transfiera el mismo no es precisamente la intención de nuestro grupo

sería bueno analizar en este momento la realidad del seguro agrario en euskadi para que nos hagamos una composición de lugar de lo que es realmente

así como analizar el modo óptimo de aplicar ese referido artículo de la ley

por ejemplo en los cultivos extensivos si bien solo el veintisiete por ciento de las explotaciones de cereales estaba asegurada esto suponía el ochenta y tres por ciento de la superficie en viñedo

lo que es solo el veintinueve por ciento de la superficie en frutales y en invernaderos

si hablamos de ganadería están asegurados el treinta y cinco por ciento en bovino el dieciocho en ovino y el dos por ciento en equino el coste total de todos estos seguros a año dos mil diez fue de cuatro millónes ciento sesenta y nueve mil euros

en esta y esta es el primer error de su intervención señora lópez de ocariz

estos seguros con un millón cuatrocientos sesenta y dos mil euros y las subvenciones

lo cual supuso que el sector agrario para asegurar su superficie y su ganado puso de su bolsillo dos millónes trescientos noventa y tres mil euros

la subvención media de la doble capa subvencional

como se ve a pesar de las ayudas recibidas que no son bajas el cuarenta y dos coma seis por ciento

en definitiva demasiadas explotaciones y demasiados agricultores y agricultoras

es por esto que la propuesta de resolución presentada por un lado evidentemente ratifica la demanda antigua que por antigua que sea es una demanda que se actualiza a día de hoy

mientras que por otra parte solicita mientras esa transferencia se produce trabajar conjuntamente con las diputaciones forales gestoras últimas de la competencia y el sector para poder desarrollar acciones

entre los que más habría que resaltar es precisamente el impulso

llegar a mucho más porcentaje de agricultores y ganaderos de lo que ahora llega para incrementar los porcentajes

también se referencia una transacción a las entidades de ayuda mutua a que se ha el señor lazarobaster que son los auténticos orígenes del seguro agrario

técnica y administrativa por otro lado se apuesta por una modalidad que es la de garantía de rentas es una modalidad cada vez más frecuente en europa

la renta de cada explotación y se trata de desarrollar el artículo ochenta y dos el siguiente que también habla de seguros y que también necesita su cariño que tiene su corazón ese artículo y lo que intentamos en nuestra

de impulsar el seguro de rentas que seguramente

de demandar la falta de conclusión de un estatuto desde hace treinta y cuatro años y al tiempo al dar cumplimiento a una ley propia

así como dedicar esfuerzo a su innovación en la búsqueda

y coger bríos para un camino innovador no se trata de aceptar el estatus actual y actuar como región subvencionadora de decisiones estatales
se trata de abrir nuevos caminos que además sean propios muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

la disposición que ha tenido a la hora de hacer su enmienda y de

la iniciativa presentada por nuestro grupo señor tellería le agradezco su intervención

es la comunidad autónoma donde menor implantación de seguros agrarios hay en este momento y es donde nos encontramos con causas que hoy no están cubiertas y que es necesario cubrirlas hablaba usted de que las diputaciones

las gestoras últimas de los seguro efectivamente son las gestoras últimas no las aportadoras de

cosa que le corresponde a la comunidad autónoma y que no lo hace y que lo hacen las diputaciones eso es lo que están haciendo las diputaciones porque ustedes

no lo hace y que no les corresponde les corresponde gestionar no

esa es la gran deuda y el gran déficit que tiene este gobierno con las diputaciones forales y con el sector primario

por lo tanto esa es la realidad y como le decía ustedes se escudan en lo de siempre en que

es porque ustedes no han puesto ningún interés y eso se transferirá como le ha dicho el señor bixen itxaso les interese hoy por hoy no les interesa no les ha interesado en estos treinta y cuatro años no

agricultora ganadero ganadera bezalako terminoak baina

era conocida existía y que además se auspicia desde los poderes públicos pero me interesa sobre todo poner la atención en esta segunda parte en la cuestión

con mayor énfasis que es la cuestión de la transferencia pendiente yo he hecho un reproche acerca de que esta pretensión

que cuando quiere llevar a cabo una transferencia pendiente sobre todo una de esta naturaleza

lo puede hacer es verdad que ahora en madrid hay mayorías absolutas que a lo mejor

intercambio de impresiones pero estoy seguro que el partido nacionalista vasco puede ejercer buenos oficios para llevar a cabo esa transferencia pero sobre todo señor tellería

lo que me confirma que eso en realidad no es más que una fórmula

gestionar este trámite es que el gobierno el gobierno del partido nacionalista vasco el gobierno del señor

en el proyecto de presupuestos que ha presentado a este cámara

dice exactamente esto con relación a los seguros agrarios se continuará con la labor de interlocución entre enesa y las diputaciones forales

a las necesidades de las personas dedicadas a la producción

no parece que este asunto esté necesariamente pendiente de la transferencia y que el gobierno actual

en estos momentos es suficiente porque lo que plantea en su proyecto de presupuestos que tiene vocación de ley es exactamente esto que le he leído

del propio presupuesto por lo tanto sinceramente o sea

nada que objetar ningún rechazo a eso pero nos parece un argumento recurrente traerlo aquí con un asunto en el cual lo que se está pretendiendo es desarrollar

de política agraria que necesita desarrollo pero

como el último turno no es mío y a lo mejor tengo que escuchar como escuché en cierta ocasión hablando de estos temas porque mi vuelta al campo no está siendo tan idílica como pensaba voy a

la ley vasca de política agraria decreto quinientos quince de dos mil nueve de veintidós de

sanitarias y ambientales para las explotaciones ganaderas decreto doscientos treinta y uno barra dos mil diez por el que se crea y regula la mesa de sanidad forestal decreto ciento cincuenta y siete barra dos mil diez de ocho de junio por el que se regula la composición y el régimen de funcionamiento del foro de innovación agraria y alimentaria decreto doscientos tres

del registro general de explotaciones agrarias decreto noventa y tres barra dos mil once del diez de mayo por el que se crea y regula el registro de entidades de control y certificación de productos agrarios y alimentarios de la comunidad autónoma decreto doscientos diez barra dos mil doce de dieciséis de octubre de reconocimiento e inscripción en el censo de las asociaciones agrarias y alimentarias representativas de la comunidad autónoma decreto ciento noventa y tres barra dos mil doce

decreto ciento veintiséis barra dos mil doce sobre la producción artesanal alimentaria de euskadi y decreto cuarenta y cuatro barra dos mil doce por el que se regula y se crea el consejo agrario esto es más que nada

que no se ha desarrollado la ley al menos en la legislatura pasada se ha desarrollado en todos estos aspectos ya sé que es una argumentación preventiva pero como ya

me adelanto a decir que esto es lo que se ha desarrollado si hay más cosas por desarrollar esas son

pero ha habido un trabajo de desarrollo de la ley se ha gestionado los seguros agrarios de la misma manera que el proyecto de presupuestos plantea seguir haciendo en el futuro

traspasarlas cuanto antes creemos que es un argumento recurrente para salir del paso en esta cuestión nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak

bien es ya la última intervención del día no se preocupen voy a terminar rápido de todas maneras señor itxaso

desarrollaron cosas pero les faltaron y la ley sabe lo que decía en su disposición final esta ley se desarrollará en un año

la señora lópez de ocariz ya irá sacando proposiciones no de ley

sobre la triple capa de seguro si ustedes lo que van buscando es que el gobierno

sí alucino en colores en un tema que nos digan que la culpa de no transferir una cosa aprobada en el estatuto de autonomía sea del pnv y que además nos digan no solo que es culpa nuestra que es la disculpa para no hacer cosas alucinante pero bueno si ustedes creen que es así

pero es que es una ley orgánica es una ley orgánica y cuando ustedes estuvieron en el gobierno vasco y en el gobierno central podían haberlo hecho también

ya no les voy a echar la culpa pero no me echen a mí la culpa de no haberlo transferido en treinta y cuatro años

que no es lo que dice la ley de política agraria alimentaria no dice que se haga un plan de seguros agrarios combinados

para impulsar temas de seguros con lo cual ustedes no están pidiendo que se desarrolle la ley están pidiendo que hagamos lo que hace el ministro cañete cada año en madrid y

el gobierno vasco con el pnv al frente reclamó esa competencia

no les voy a decir lo que nos dijo con palabras jurídicas pero lo que nos dijo y seguimos reclamando esa competencia pero intentar ya lo hemos intentado que lo sepa y el final

nos piden que presupuestemos yo les voy a decir una cosa especialmente a usted señor itxaso y al grupo socialista ojalá para los seguros agrarios
podamos presupuestar muchas gracias eskerrik asko